berrikuntza dauden plan honetan la principal novedad de este plan

conceptos nuevos así como de nuevos destinos a las ayudas económicas a la rehabilitación en euskadi continuando con el plan que ya se venía realizando anteriormente nuevos conceptos

integral a los planes renove porque contemplan de manera integrada además de las tradicionales ayudas a la rehabilitación

a la inversión en medidas de ahorro energético y reducción de emisiones de ce o dos y ayudas a la mejora de la accesibilidad

es decir cumplen un objetivo múltiple mejorar las condiciones de vida de miles de familias mejorar la accesibilidad de nuestros edificios

para personas con movilidad reducida contribuir a un modelo de vida más sostenible y generar también actividad económica y trabajo en un sector que ha sido duramente castigado por la crisis y unido a ello

proveniente de esa relajación del déficit que nos va a posibilitar destinar más recursos a profundizar

sobre todo en las viviendas anteriores a mil novecientos setenta y nueve durante años tanto desde el ámbito público como del privado se ha incidido más en la nueva edificación

y las comunidades de vecinos tampoco han estado sensibilizadas en la materia la asunción de los compromisos de reducción en un veinte por ciento de las emisiones de ce o dos

reducción del veinte por ciento del consumo energético y de un incremento del veinte por ciento de las energías renovables para el año dos mil veinte es necesaria para llegar a esos objetivos

también es necesaria esta intervención desde una perspectiva de carácter socio sanitario porque la mejora de la accesibilidad de la envolvente térmica y de los entornos urbanos conlleva una mayor autonomía y una significativa reducción de las necesidades de atención a las personas que pueden estar en una situación de dependencia

renove en la movilización de inversión privada en el empleo y en el comercio y en la industria relacionadas es ya conocido

el programa de ayudas en materia de accesibilidad a ayuntamientos y entidades locales menores y el programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios para la elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio edificado con este plan pretendemos alcanzar a un total de cincuenta y dos mil viviendas a lo largo del periodo

además de otorgar ayudas por un importe de ochenta y uno coma cinco millónes de euros en el periodo dos mil trece dos mil dieciséis que movilizará así mismo ochocientos cincuenta y nueve millónes de euros privados totalizando novecientos cuarenta y uno millónes de euros

y tendrá un retorno fiscal en el periodo dos mil trece dos mil dieciséis de doscientos ochenta y dos coma tres

habida cuenta que en la legislatura anterior se trajeron varios planes renove a este parlamento queríamos saber qué novedades y ventajas supondrá el plan renove rehabilitación

las explicaciones del señor consejero nos han parecido muy claras compartimos con el señor aburto las líneas generales del plan renove rehabilitación y queremos

el plan renove se encuadra dentro del programa de reactivación del empleo de hecho

que uno de los sectores que más ha sufrido los efectos de la crisis es el de la construcción habiendo desaparecido tres de cada diez empleos desde el año dos mil ocho

todas las medidas y esfuerzos dirigidos a generar empleo en este sector tan castigado bienvenidas sean bestalde aipagarria iruditzen zaigu

eta gizarteari oro har creemos que existe un abanico importante de actuaciones a desarrollar respecto a la rehabilitación y reforma de viviendas que además de generar empleo

también las medidas tendentes a facilitar la accesibilidad mejoran el bienestar de las personas más vulnerables

es aprovechar esta oportunidad de la flexibilización lo vamos a hacer para impulsar las políticas de estímulo a la actividad económica para favorecer inversiones que generen

y es una oportunidad para que el gobierno pero también las diputaciones forales y eudel pongamos en marcha nuevos proyectos que generan actividad y empleo el gobierno ha puesto sobre la mesa doscientos cuarenta y cinco millónes de euros esto significa poder incrementar más de un veinte por ciento la inversión

bi aste honen gainean ere galdetu nuen le dirigí una pregunta al lehendakari sobre el déficit

iba a proponer para qué lo utilizaría dónde se tomaría la decisión definitiva y sobre todo con quién iba a contar para tomar esa decisión

y propuestas y seguidamente espetaba que en treinta años aquí ha habido dos modelos

un modelo que construye y que otro destruye una respuesta que se salía un poco de la pregunta que yo hacía pero realmente tengo que reconocer que sí que aquí hay dos modelos un modelo de corte liberal que es el que se ha estado aplicando durante treinta años por el partido nacionalista vasco y un modelo de corte social

en el modelo de corte liberal la sociedad es jerarquizada y es vertical frente a un modelo de corte horizontal e igualitario que tiene la ideología social

de corte liberal no existen canales de participación frente al otro modelo que tiene como prioridad establecer la participación ciudadana

que está planteando que hay que proteger al débil un modelo que tiene como referente principal único la sociedad

podemos debatir sobre conceptos teóricos sobre el modelo liberal sobre el modelo social sobre el modelo socialdemócrata sobre el modelo socialista en todo caso más allá de lo que es el debate teórico yo creo que lo importante para los ciudadanos y ciudadanas vascas es

y la práctica que se ha seguido desde las instituciones vascas lideradas por el partido nacionalista vasco en concurso también con otras formaciones políticas en coaliciones de gobierno que hemos tenido también desde el partido nacionalista vasco con otras formaciones políticas

tener presentes en lo que ha sido el modelo de construcción social que se ha caracterizado también en la comunidad autónoma del país vasco

plantea de modelos teóricos en cuanto a lo que es el modelo liberal y si alguien ha sido si alguien ha sido crítico con lo que es el modelo hasta ahora seguido desde las instituciones europeas ha sido también el partido nacionalista vasco en la reivindicación de la necesidad de compensar

de estímulo para la reactivación de la economía señora mintegi podemos debatir sobre lo que es europa yo insisto creo que

y el gobierno vasco se caracteriza por una reivindicación de más europa porque fuera de europa hace mucho frío y de más europa y de una europa de las personas eskerrik asko

buenos días a todos y a todas hace un par de semanas la consejera de desarrollo económico y competitividad negó que la implantación de la tasa turística estuviese en la agenda del gobierno vasco

declaraba públicamente que no descartaba implantar dicha tasa en el territorio histórico de gipuzkoa al ser esta una cuestión que se encontraba muy trabajada aunque dichas declaraciones hayan sido desmentidas por su propio gobierno foral señalando que el tema estaba aún bastante verde

hay dos versiones dos versiones de dos instituciones con distintas responsabilidades que en el desarrollo de sus competencias tienen intenciones divergentes sobre la implantación

estamos por lo tanto señorías ante una ceremonia de la confusión porque institucionalmente se toman decisiones contrapuestas que afectan al sector turístico en general

crudeza y virulencia por la disminución del consumo y del gasto y que se encuentra con que las instituciones no solo no son capaces de fijar actuaciones que impulsen y favorezcan de forma determinante el desarrollo del sector

dicho de otro modo nos encontramos por un lado con que el gobierno debe fijar la ordenación turística y por otro con que una diputación foral pretende hacer uso

entre el gobierno y la diputación personas trabajadores y empresarios

de las instituciones a los socialistas nos parece que esta situación es un verdadero despropósito creemos que el gobierno debe abandonar su indefinición y decir con claridad cuáles son sus intenciones en esta materia por eso

sepa a que situación tendrá que atenerse en un futuro muy próximo le preguntamos señora consejera de desarrollo económico y competitividad qué efectos considera el gobierno vasco que puede tener la implantación de la tasa turística en unos territorios y no en otros muchas gracias

y en primer lugar señora corcuera desde luego no sé dónde ve la indefinición del gobierno porque

el mismo ni contempla en su agenda ni en su calendario un impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos en euskadi lo puedo decir más alto más claro creo que no

con esa postura clara sin embargo también me gustaría aclarar que un impuesto de este tipo no sería en ningún caso una competencia foral

las competencias forales están establecidas por la lth que también establece que una materia

a la institución común es decir al gobierno vasco en este caso las haciendas forales derivan del concierto económico y los impuestos recaudados por las diputaciones forales

de la existencia de ese concierto y un hipotético impuesto de estas características un impuesto turístico sería de nueva creación y no estaría amparado por el concierto el gobierno vasco es el competente por tanto en materia de turismo y este impuesto no sería no sería un impuesto concertado y en ningún caso sería propio de las diputaciones forales ni indefinición ni incertidumbre para el sector sería en su caso un impuesto de la hacienda general del país vasco es decir del gobierno vasco por tanto

no parece tener demasiado soporte la idea de un impuesto turístico en un único territorio finalmente llegado a ese hipotético caso que repito no es está en este momento en la agenda del gobierno

es clara respecto a dos temas la implantación en un solo territorio tendría un efecto de distorsión absoluto y consideramos que se debe tender a una homogeneización como en otros impuestos en los tres territorios

y tratos discriminatorios entre los territorios no hay base competencial para una aplicación unilateral en uno de los territorios y sería un error

y el atractivo de nuestro sector turístico beraz jaurlaritzak ez dauka bere agendan ezartzea une honetan eta

bien señora consejera nos alegramos señora consejera de que la respuesta

el panorama sobre todo porque en los cuatro primeros meses de este año el número de personas que visitan euskadi

en la tasa interanual ha sido de un veinte por ciento y por lo tanto quienes trabajan en el sector turístico y hotelero están haciendo grandes esfuerzos

contra estos datos por eso no era de recibo que en este contexto desde las instituciones

contrapuestos tampoco resultaba especialmente clara ni solventaba las dudas la respuesta que usted me dio por escrito a una pregunta que también le realicé cuando me dijo que estaba recabando información sobre una tasa que a la vez consideraba que era desincentivadora por tanto si no le servía la tasa para qué se interesaba por ella y si se interesaba por ella cómo es que no estaba en la agenda del gobierno aclarado y solventada la situación esperemos que le haga usted llevar también a las diputaciones cuál era la posición del gobierno

no implantar una tasa y ejercer las competencias que como gobierno tiene el propio gobierno vasco señora consejera bastante tiene los profesionales del turismo y del sector hotelero con sortear y hacer frente a esta dura crisis económica que padecemos

les atrapásemos en esa indefinición de las instituciones muchas gracias

zerga hau es obligación del gobierno conocer qué ocurre con sus competencias en otros lugares y entre todas las reuniones que estamos manteniendo evidentemente también lo hemos hecho con cataluña las realidades son bien diferentes y como usted bien dice en este momento consideramos que

en contra del sector ni para hacer algo

zurea da hitza gracias señora presidenta señor lehendakari los trabajadores las empresas los agentes sociales los partidos políticos
el conjunto de la ciudadanía y los gobernantes en particular

compleja y exigente esta situación obliga al conjunto de los actores sociales económicos y políticos a replantearse sus tradicionales formas de actuación para encarar situaciones novedosas y complejas en estos momentos de dificultad la acción pública debería estar a la altura de los retos que se presentan

demostrar que es esencial su papel y sirve para tejer una sociedad fuerte con un gobierno competitivo capaz de generar las condiciones para hacer de euskadi un lugar más atractivo desde el punto de vista económico de lo que actualmente es

las condiciones para el crecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad trabajando conforme a las nuevas realidades la política debería también generar valor añadido

miopías de corto alcance y proyectar una acción común que sirva que sea eficaz que nos sitúe en la realidad de una euskadi más competitiva la política de pacto de consenso tiene hoy más sentido que nunca deberíamos mirar al futuro y no parchear solo el presente procurando un entendimiento ante la grave situación de crisis el desencanto social y la envergadura de un futuro complejo

por eso señor lehendakari le parece que su gobierno en minoría puede garantizar la gestión de esta crisis económica los retos de presente y futuro en euskadi muchas gracias

señora quiroga la puerta está abierta para acordar los tres ejes de futuro de este país de presente y de futuro reactivación económica y empleo

o entregué en mano a los líderes de los grupos parlamentarios de las formaciones políticas con grupos parlamentarios una propuesta de acuerdo presupuestario

sabe usted lo que dijo el señor basagoiti perfectamente al entregarle la propuesta que le hice llegar en mano lo que dijo el señor

inmediatamente dijo que era públicamente además lo dijo que era asumible por todos los partidos asumible asúmalo señora quiroga la puerta está abierta ahora bien mientras usted se decide a entrar o

o a plantear alternativas negociarlas acordarlas este gobierno

va a seguir actuando y vamos a seguir respondiendo a los retos de este país este gobierno ha comprometido doscientos cuarenta y cinco millónes de euros

estimular la economía ya no me refiero a los programas suscritos con entidades financieras

lo que ha hecho el propio gobierno ha sido cuarenta y dos millónes de euros para ayudar a las medianas y pequeñas empresas a abrirse a nuevos mercados

el sector de la rehabilitación de edificios veintidós millónes de euros en el plan renove energético este gobierno ha puesto sobre la mesa veinte millónes para inversiones en vitoria gasteiz con estas y otras medidas este gobierno responde a la crisis este gobierno en minoría activa los recursos a su disposición para responder a las urgencias del presente y a las necesidades del futuro

sumando en todo caso nosotros vamos a seguir sumando

son del orden de cuatrocientos diez millónes de euros este último mes hechos por este gobierno en minoría eskerrik asko

a su gobierno le han entrado ciertas prisas para abordar un problema importante

que afecta a la gobernabilidad de los vascos es decir que su gobierno en minoría no es capaz no puede garantizar la estabilidad necesaria para encarar una legislatura compleja

un proceso de negociación con el partido socialista de euskadi lo que trasciende esas reuniones es que pese a que usted ha dado aquí unas cifras necesitan recaudar más

más de los ciudadanos por tanto lo que estamos viendo es un acuerdo de políticos para políticos para no tener que entrar en un ajuste que usted sabe que es necesario de la administración

en un momento como este este es el mejor momento para que un gobierno vaya más allá su principal reto es generar las condiciones para el crecimiento económico de euskadi

ahora que podemos y debemos afrontar la realidad de un nuevo mundo porque aquel sobre el que se tejían aquellos acuerdos entre nacionalistas y socialistas no es el mundo de hoy

a un acuerdo global amplio y trabajado un acuerdo diseñado para que euskadi afronte con las mejores garantías un futuro distinto

nuestra visión de euskadi nuestra capacidad de influencia

durante siglos nos hemos desarrollado formando parte de españa con discrepancias pero también con grandes acuerdos con proyectos comunes con empresas sociales culturales y económicas

al desarrollo común eso es lo que nosotros le proponemos para llevar a cabo una propuesta seria

de los vascos señor lehendakari piénselo muchísimas gracias

la respuesta a la crisis señora quiroga necesita acuerdos sí sin duda pero sobre todo necesita acción esa acción de la que me acusaba a mí de inacción durante tantos plenos y que ahora sin embargo me reprocha la urgencia o las premuras que tenemos en cuanto a todas las acciones que llevamos a cabo de este gobierno en minoría este gobierno va a seguir

decisiones y entre otras muchas he citado las cinco iniciativas últimas de este último mes el gobierno en minoría mira por euskadi me hace referencia usted a los pactos durante siglos

en mayoría también lo haga le doy ejemplos que he propuesto al presidente rajoy el tren de alta velocidad el concierto el cupo foronda donostia dos mil dieciséis la convivencia la educación etcétera podría seguir

señor lehendakari ayer eh bildu y el partido nacionalista vasco unieron sus votos para promover la derogación del veinticinco de octubre

le pregunto por la opinión que tiene su gobierno sobre este asunto hoy porque efectivamente conocemos cuál era la opinión de su gobierno hace exactamente catorce días

en nombre del gobierno vasco decía lo siguiente se produciría división en el caso de promover su derogación este debate genera nuevamente división traslada a la sociedad un mensaje de conflicto da la impresión

a los ciudadanos sino que se los creamos no creemos que sea el momento de reabrir de cara al año dos mil catorce un nuevo debate que creemos que no conecta en estos momentos directamente con las necesidades que tiene la sociedad porque decía hacer un debate público para derogar esa ley llevaría a evidenciar nuevamente la diferencia y el desacuerdo esto decía el gobierno hace dos semanas ayer sin embargo su grupo parlamentario efectivamente la división al promover la derogación del día de euskadi trasladó a la sociedad un mensaje de conflicto y generó un debate que no conecta con las necesidades que tiene la sociedad fomentó la diferencia y el desacuerdo

señor lehendakari está usted de acuerdo con lo que dijo su gobierno hace quince días o está usted de acuerdo con lo que dijo ayer su grupo parlamentario

hace dos semanas en esta misma cámara la posición del gobierno se resume en las tres palabras claves para mí de su intervención no prioridad consenso y

el gobierno dijo y mantiene que este no es un tema prioritario para el gobierno el gobierno dijo y mantiene que es partidario del consenso en relación a esta materia

que respeta y respetará las decisiones de esta cámara esta es la posición del consejero esta es la posición del gobierno eskerrik asko

gracias lehendakari es decir que usted no está de acuerdo con lo que planteó ayer y con lo que defendió ayer su grupo parlamentario

su grupo parlamentario porque efectivamente ayer su grupo parlamentario

aburto efectivamente lo que hizo fue fomentar crear crispación y crear conflicto lo cierto señor lehendakari es que ustedes su grupo parlamentario el partido nacionalista vasco han sucumbido

de eh bildu no han podido soportar su presión y por lo tanto han cambiado de criterio y deprisa y corriendo presentaron esa proposición de ley

esa es la realidad señor lehendakari qué problema usted en que los vascos celebremos como día de euskadi el día de la aprobación del estatuto de gernika qué problema usted en ello es nuestro marco de convivencia aquello que nos permite vivir juntos y aquello que junto con la constitución española efectivamente

es aquello que nos une a los vascos vascos diferentes con diferentes ideologías qué problema hay en defender su vigencia y defender la vigencia de esa festividad no terminamos de entenderlo

con la posición política del grupo nacionalistas vascos lo que hacen es denigrar el estatuto de gernika gracias al cual ustedes han gobernado casi siempre

este parlamento gracias al cual usted es hoy lehendakari por lo tanto abogan por la confrontación y por el desencuentro

un grave error y tenemos que decirlo gracias

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mire señor maneiro yo creo a mi modo de ver por lo menos que en este asunto se debaten dos cuestiones diferentes la primera es el respeto hacia el estatuto de gernika señor maneiro usted

cuando plantea la supresión del concierto económico la supresión de los territorios históricos etcétera

y la segunda es la declaración de un día de euskadi y como usted recurre a las palabras literales del consejero le recuerdo lo que dijo el señor aburto creemos que el estatuto de gernika ha sido y es un instrumento de desarrollo de bienestar y de crecimiento como pueblo y sociedad esto significa respeto al estatuto señor maneiro

hay muchas mejores maneras de mostrar respeto hacia el estatuto que declarando un día de fiesta con cumplirlo o intentar que el estado lo cumpla sería más que suficiente esto es respeto también a las decisiones de euskadi y en euskadi

no lo hay este parlamento aprobó una proposición de ley y es posible que ahora debata otra proposición de ley presentada por grupo parlamentario si hay grupos parlamentarios dispuestos a promover un cambio en el parlamento el gobierno no tiene nada que objetar

esta proposición de ley nació del propio parlamento y no del gobierno la que hoy es vigente

no nació del gobierno anterior sino de una proposición de ley tiene lógica por lo tanto que sea el parlamento quien impulse los cambios que estime oportunos

o modificarla el gobierno la aplicará habla usted de división señor maneiro de crear problemas de conflicto quiero recordarle que este debate no comenzó ayer este debate tampoco comenzó el veintidós de abril del año dos mil diez ya viene de legislaturas anteriores ya ha habido una pretensión en legislaturas anteriores

nos habla se lo debemos a usted también y a quienes presentaron aquella proposición el veintidós de abril del año dos mil diez si alguien ha cambiado aquí de criterio es usted

el año dos mil diez pretende relevar ahora al infierno de la desdicha la misma cuestión señor maneiro

a usted señor maneiro le gusta más la fiesta del estatuto que el propio estatuto no digo que no lo respete simplemente digo que si estuviera en su mano lo vaciaría de contenido

lo realmente útil sería que usted y todos y cada uno de los grupos de esta cámara
defendiesemos el cumplimiento del estatuto en madrid y no una fiesta en euskadi eskerrik asko

señoras y señores parlamentarios señor lehendakari miembros del gobierno quiero señor urkullu plantear esta iniciativa desde la más estricta constructivos yo no quiero desde luego establecer

el camino en relación con la materia que vamos a abordar de cooperación al desarrollo y hablamos también en ese sentido al hablar de cooperación al desarrollo de nuestras propias posibilidades de nuestras propias prioridades como país ya más en lo ético o lo importante en

oportunidad en cualquier pleno próximo de debatir iniciativas

mociones que pueden estar sobre la mesa sobre solidaridad sobre cooperación

pero hoy nosotros entendemos que es necesario que el lehendakari bajo cuya batuta se mueve precisamente la dirección la política de cooperación al desarrollo despeje dudas y pueda establecer los compromisos o prioridades en relación con esta materia

hemos tenido muchos encuentros también las comisiones la comisión de derechos humanos de este parlamento y de acción exterior esos encuentros y en esas tres declaraciones pues se han manifestado la preocupación

cooperación vasca al desarrollo nosotros presentamos esta iniciativa hace tiempo lo presentamos

mantiene absolutamente toda la vigencia nosotros cuando presentamos la iniciativa estábamos asistiendo con preocupación al anuncio de la brusca disminución de la partida presupuestaria destinada a cooperación vasca para el desarrollo

entre otras organizaciones con la coordinadora de ongs de euskadi entonces nos hizo llegar el recorte anunciado en aquel momento por lehendakaritza y por la agencia vasca de cooperación que era un recorte radical y afectando seriamente a las convocatorias del focad y los proyectos

efectivamente en el proyecto de presupuestos y

de crisis y de graves problemas para esa inmensa mayoría de organizaciones no gubernamentales

una posible desaparición en relación con el escenario y el panorama que se planteaba

y un merecido reconocimiento y entonces en ese momento parece que todo eso corría el riesgo

sigue ahí y por eso nosotros esa iniciativa o esta

vamos a tener próximamente debates sobre esta materia

polo ortega el director de la agencia vasca de cooperación al desarrollo pues compareció

de dos mil trece y efectivamente fue una comparecencia interesante

de presentación ante el parlamento fue más formal que entrar bastante en el fondo del asunto desde entonces han pasado cosas

dos mil trece con el importante recorte en los gastos de cooperación al desarrollo que mantenían en la zozobra a muchas

vascas de desarrollo y a otros agentes también que

bien con posterioridad la retirada del proyecto de cuentas para el dos mil trece pues hizo que lo relativo a las aportaciones económicas para las diferentes secciones y estructuras departamentales hubieran que ubicarse en el presupuesto prorrogado de dos mil doce

explicaciones eso debe de ser explicado y eso

cuestión de la cooperación al desarrollo sino en otras muchas donde

la consideración que el gobierno vasco y su lehendakari hace de la cooperación al desarrollo euskadi ha sido una referencia para la cooperación al desarrollo en españa y fuera de españa en euskadi se ha materializado una cultura de cooperación al desarrollo interesante y que este parlamento también

no gubernamentales y otros agentes que se han especializado desde la experiencia y que son capaces de exportar un modelo útil

gobierno otras instituciones forales locales han hecho importantes esfuerzos importantes aportaciones también para ello entre otras la cooperación

latinoamericanas pues sigue siendo una referencia eso es así y nosotros entendemos que es necesario mantener el esfuerzo

se explique sobre los propósitos en esta materia la prórroga demuestra que hay un marco de actuación pero también su gestión se mueve muchas veces en esa

usted nos hable de sus prioridades sobre cooperación al desarrollo es para nosotros importante es decir esta iniciativa mantiene plena vigencia

un debate parlamentario sobre esta cuestión y en ese sentido es necesario

de su señoría en relación a esta materia muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

señor barrio usted ha hecho mención a la comparecencia del director de la agencia vasca de cooperación y es cierto el día seis de marzo el propio director compareció ante la comisión del parlamento para dar cuenta de las líneas estratégicas de actuación

en ningún momento hemos ocultado la situación todo lo contrario la hemos afrontado con claridad la hemos afrontado con transparencia usted conoce perfectamente

este ejercicio presupuestario aún cuando se ha prorrogado del ejercicio anterior hemos dicho que no vamos a gastar más de lo que tenemos ahora bien usted conoce también

en el ejercicio presupuestario de este año comenzaré por la visión del conjunto de la legislatura motivo inicial de su interpelación señor barrio el gobierno vasco se ha comprometido a recuperar las magnitudes financieras destinadas a la cooperación es un compromiso señor barrio se lo aseguro

me aceptará usted señor barrio que le recuerde que en estos ejercicios precedentes se aprobaron presupuestos deficitarios presupuestos deficitarios

recuperaremos los mismos niveles de ayuda económica la única diferencia es que lo haremos con un presupuesto riguroso me interpela también sobre el presente año le voy a dar traslado del mismo dato que se ofreció en este parlamento el referido día seis de marzo por parte del director de la agencia vasca de cooperación

están vigentes el presente año todos la dotación económica no es la misma sí no es la misma pero es evidente que la gestión presupuestaria va a tener que ser

por ambas partes pero insisto todos los proyectos del pasado año

en relación a este mismo año dos mil trece un último dato importante este gobierno va a cumplir todos los compromisos adquiridos en ejercicios presupuestarios anteriores

nuestros compromisos hemos afrontado este tema con realismo y el gobierno ha ofrecido toda la información tanto en este parlamento como directamente a los agentes de cooperación al desarrollo no hemos eludido la relación con los afectados todo lo contrario usted hacía referencia señor barrio

pues bien el director de la agencia vasca de cooperación se ha reunido

con las que ha mantenido más de un centenar de reuniones técnicas hemos planteado la situación insisto con total realismo y transparencia a la coordinadora

nos encontramos en relación permanente desde el primer día y hemos mantenido seis

hemos organizado una reunión en cada uno de los tres territorios históricos para exponer la situación real del ejercicio presupuestario de este año dos mil trece en estas reuniones han participado noventa y dos organizaciones y hemos recibido aportaciones de quince de ellas la interlocución e información al sector por lo tanto por parte del propio gobierno ha sido permanente quiero recordarle

el mismo mes de diciembre del pasado año este gobierno firmó un convenio plurianual

euros destinados a financiar las actividades de esta asociación como agente de transformación y sensibilización

berreskuratu egingo dugu usted conoce la realidad sabe perfectamente que el gobierno ha pasado

a contar si no vamos a gastar más de lo que tenemos con

este gobierno ha afrontado esta situación con realismo y con verdad hemos realizado un ejercicio

todos los sectores tendrán que hacer en esta situación que nos afecta a todos hemos tenido que adoptar decisiones que no se adoptaron en el momento en que debería de haberse hecho y usted lo sabe bien conoce por lo tanto lo que es la

y le pido en este sentido que sea también consciente del esfuerzo de priorización que por el momento tenemos que hacer con ese compromiso manifestado de recuperar para final de esta legislatura las magnitudes

la cooperación al desarrollo compromiso que este gobierno tiene en la primera línea de su quehacer y de su actuación eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

desde luego hacer de esta iniciativa una iniciativa contenciosa

o insatisfactoria sus explicaciones yo creo que tendrá que ser algo que vayamos viendo y por la que vayamos caminando

que algunos temas en los que podamos discrepar incluso abiertamente pero en este tema lo que nosotros y lo que mi grupo quiere decirle es que nosotros lo que queremos es ayudar al gobierno

situación de recorte que previsiblemente tenga su arreglo

entre tanto son tres años y pico lo que puede llegar hasta el final de legislatura

de respaldo presupuestario a lo que hoy tenemos o sea que entre tanto hay una preocupación

de todo tipo que influyen que trabajan en la cooperación al desarrollo usted ya ha dicho que pues mantener los compromisos de años anteriores pero lógicamente hay un tiempo

en el que parece que vamos a estar en un pequeño momento complicado pero en ese sentido yo quiero agradecerle el propósito de mejorar en el futuro pero también le quiero decir que igual hay que hacer un planteamiento

en relación con esta cuestión y nosotros queremos decirle que aportaremos constructivamente y ayudaremos

no políticas sino de referencias éticas de referencias de solidaridad usted mismo en una respuesta al señor maneiro en relación con la cooperación

ideológico e instrumental de la cooperación para el desarrollo efectivamente estamos hablando otra vez de solidaridad de derechos humanos y esa es la cuestión fundamental y de nuestro papel el motor vasco en relación con esta cuestión así que nosotros colaboraremos para mejorar también haremos

de esta interpelación pues seguramente saldrá también alguna moción

que se instalará seguramente en otras iniciativas parlamentarias que ya están presentadas y tramitadas

queremos eso ayudar al gobierno a hacer un enfoque realista de la situación porque también hemos visto

las organizaciones no gubernamentales en sus coordinadores usted hablaba efectivamente de la firma de un acuerdo plurianual pero también vimos nosotros la preocupación

elaboró una carta precisamente remitida al lehendakari

en el que reclamaba también al gobierno algunas rectificaciones algunas reconsideraciones en el que hacía un análisis de la situación en la que muchas entidades o muchas organizaciones no gubernamentales

y eso efectivamente el planteamiento de preocupación parece que se va a mantener desde ahora hasta ese

la integridad de nuestra cooperación al desarrollo que será al final de la legislatura por eso

declaración de asamblea de trabajadores y de trabajadoras del sector de la cooperación al desarrollo que manifiestan esa preocupación en cualquier caso yo creo que hablaremos de eso

es un periodo demasiado largo para entender que ese sea el objetivo

que tendrá todo nuestro apoyo para ese cuestión porque es una cuestión de país

le agradezco señor barrio el tono de su intervención y la disposición a aportar y la disposición

el compromiso de este gobierno supone de cooperación al desarrollo yo creo que este es un tema delicado en cuanto que hablemos también la prestación de la cooperación de ayuda al desarrollo un tema delicado en el que

a lo que usted ha hecho referencia en cuanto a los trabajadores trabajadoras de determinadas organizaciones porque eso me llevaría a un debate sobre la concepción del

de los proyectos o de las estructuras dentro de lo que puedan ser determinadas organizaciones y no quiero entrar en ese tema me pregunta usted que sí que bien que en relación al compromiso de este gobierno para el final de la legislatura y entre tanto qué entre tanto

ese orden de prioridades que tenemos que establecer con menos recursos de los que disponíamos hasta ahora y con menos capacidad de endeudamiento dentro de ese orden de prioridades señor barrio entenderá usted que lo primero para este gobierno es garantizar los servicios esenciales para el bienestar y el desarrollo de los vascos y vascas como mejor garantía

que vivimos y es una priorización que también todo tipo de sectores tendrá que hacer beraz eusko jaurlaritzaren jarrera hasieratik egin diogu aurre gai honi errealismoz

planteamiento que sí quiero subrayar es que el compromiso del gobierno ante lo que usted mostrando su disposición reitera la

se mantiene por parte del gobierno vasco lo hemos demostrado en la presentación de las líneas estratégicas de cooperación para el conjunto de la legislatura que se han presentado en este mismo parlamento vamos a adoptar decisiones que nos permitan mantener el compromiso con la cooperación para el conjunto de la legislatura

mantentzeko legegintzaldi osoan por último la situación económica

es difícil sí para todos y para la propia agencia de cooperación para el desarrollo también que ha adoptado medidas para afrontar esta nueva etapa y sí querría dejar esta señal en esta intervención en cuanto a lo que son las medidas adoptadas por la propia agencia de cooperación

tan exigente consigo misma como lo es con las entidades colaboradoras así

se ha planteado los siguientes objetivos para su propia gestión mejorar los protocolos de gestión económica interna iniciar un proceso de revisión de los instrumentos de cooperación plantear un nuevo sistema de seguimiento y de evaluación de los proyectos vamos a gestionar por lo tanto señor barrio con más eficiencia y más eficacia

a mejorar las gestiones de cara a lograr una mejor coordinación en las actuaciones con el resto de instituciones públicas así como con la unión europea y el comité de regiones señor barrio insisto en lo que decía al principio de esta segunda intervención agradeciendo el tono acepto también su disposición a colaborar y reconozco su sensibilidad en la cooperación al desarrollo sensibilidad que sin embargo en su propio partido en otros ámbitos del estado español

esa apelación que se hace desde el partido popular del país vasco al gobierno vasco sugeriría que proponga también en aquellas comunidades que ustedes gobiernan y también al presidente español

de cooperación al desarrollo en otras palabras que no caigamos en la tentación de señalar la paja

y tratar de ocultar la viga en el propio siendo que el gobierno vasco ha manifestado realmente cuáles son sus compromisos para toda la legislatura eskerrik asko eskerrik asko

se marca como primera prioridad el impulso al empleo juvenil ba kasu honetan aukera izan da

eta ondoren radio vitoriaren biz iraupena kolokan jarri señora breñas no es cierto como usted afirma en su interpelación o

que e i te be tiene intención de despedir a cerca del veinticinco por ciento de su plantilla de radio vitoria no es cierto

como ayer lo explicó el señor ramírez escudero es de cuarenta y ocho personas y sigue siendo de cuarenta y ocho personas sigue siendo no es cierto

o construyen ustedes esta interpelación el día trece de mayo la directora general de e i te be compareció en esta cámara y presentó su proyecto para esta legislatura

ha mantenido encuentros con todos los grupos parlamentarios ha planteado también sus propuestas en el consejo de administración de e i te be está elaborando como ayer se dijo un plan estratégico para e i te be en ningún caso en ninguno se ha cuestionado la continuidad de radio vitoria en el proyecto de e i te be en su interpelación plantea

le voy a decir una cosa que usted debería conocer señora breñas e i te be

autónomo cuya directora general ha sido nombrada por esta cámara y las relaciones entre e i te be y el gobierno vasco se establecen a través de un contrato programa

documento recoge los compromisos de servicio público de e i te be y si usted acude a ese documento comprobará que en el mismo está presente radio vitoria comprobará usted que se mantiene la marca radio vitoria con una oferta propia

que se mantiene el mismo número de horas de programación propia de radio vitoria que se mantiene el mismo nivel de calidad de los contenidos informativos y de entretenimiento que se ofrecen

radio vitoria y el servicio público que ofrece no la hay porque tanto e i te be como el gobierno vasco son partidarios de la continuidad de radio vitoria

como toda entidad pública adopte medidas para garantizar el equilibrio presupuestario de sus cuentas o no lo están haciendo todas las instituciones públicas o no lo están haciendo todos entes y organismos autónomos

esta gestión rigurosa es exigible para no poner en riesgo la viabilidad futura de la radio televisión pública vasca por eso precisamente para no poner en riesgo

hoy esta gestión prudente y responsable es sinónimo de garantía de futuro para el proyecto de e i te be y de radio vitoria en nuestro entorno estamos conociendo casos de proyectos públicos de radio de televisión que han perdido su capacidad de garantizar su viabilidad futura hemos conocido y vivido muy de cerca los problemas en radio televisión española los hemos conocido en radio televisión pública de valencia o en telemadrid

ganar en eficiencia para garantizar la sostenibilidad futura e i te be por lo tanto ha adoptado una línea de optimización y eficiencia en el uso de los recursos públicos

expresa de mantener sus compromisos de servicio público y de calidad radio vitoria forma parte inequívoca de estos compromisos de e i te be

eta ezagutuko ditugu hurrengoak ere las instituciones públicas contamos con todos los instrumentos de seguimiento y control necesarios

este mismo parlamento cuenta con una comisión específica para el seguimiento y control de e i te be por último e i te be se debe también a su consejo de administración

contamos por lo tanto con los instrumentos necesarios para garantizar la pervivencia de e i te be y de radio vitoria como servicio público expreso deseo de este parlamento
del gobierno vasco y de la propia e i te be eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna jarraian breñas andreak dauka hitza

presupuestaria de e i te be es inferior a la de los últimos años y no voy a entrar en los juegos de lo que supone la interpretación

del mantenimiento de contratos en función de si es la plantilla estructural o si es personal que trabaja para programas contratados por productora y la finalización de esos contratos de programa

en estas circunstancias de la disponibilidad presupuestaria es en las que e i te be se ha comprometido ha mantener un nivel de servicio

de la misma forma e i te be se ha comprometido también a una optimización de sus propios recursos de forma que pueda mantener ese nivel de servicio con menores recursos económicos me pregunta usted cómo se va a mantener pues con más esfuerzo claro

la continuidad de radio vitoria e i te be ha garantizado que radio vitoria es una parte relevante de su oferta radiofónica es una de sus cinco emisoras de referencia y no tiene ninguna intención de desprenderse de ella podemos afirmar todo lo contrario

garantizar la continuidad de esta emisora manteniendo las líneas generales de su programación otro aspecto que me preocupa

e i te be es un organismo de carácter público las instituciones públicas tenemos instrumentos de seguimiento y control lo he dicho antes para garantizar el servicio público de e i te be

a través de la firma de un contrato programa con el gobierno y este contrato programa establece las obligaciones del servicio público de la radio televisión pública vasca

está recogida la continuidad de radio vitoria tanto desde el punto de vista de su proyecto como de su programación señora breñas

cuenta con una comisión de seguimiento y control de e i te be todos los grupos cuentan con representación y participan en esta comisión en tercer lugar e i te be se debe también a su consejo de administración no solamente a la comisión parlamentaria lo he dicho antes también e i te be en su consejo de administración celebra sus reuniones con carácter mensual y en el mismo la directora general ha garantizado también en esa reunión la continuidad de radio vitoria

del gobierno del estado español ese l mayor ataque y la mayor agresión contra el euskera contra el currículum vasco contra el sistema educativo vasco y contra euskal herria

porque la historia de españa será una asignatura troncal con unos contenidos establecidos por el ministerio de educación

queremos españolizar cataluña honekin adieraziz

recentralización del estado y limitar nuestra capacidad para decidir en euskal herria nuestra propia educación un ataque en toda regla al euskera atenta contra nuestros derechos lingüísticos no garantizando su conocimiento ni uso y pone el camino a su desaparición

y la uniformización del estado español en definitiva

más de treinta años de escuela democrática vasca para llevarnos a otros tiempos la gravedad del momento señor lehendakari es máxima desde nuestro punto de vista

zuregandik espero dutena eso es lo que quiere escuchar la sociedad vasca señor lehendakari los agentes educativos que este gobierno
no va a aplicar la ley va a responder hoy a sus expectativas eskerrik asko eskerrik asko

hain zuzen ere orain arte gertatu egin den bezala este gobierno por lo tanto utilizará toda su capacidad normativa

tenemos que ser capaces de configurar un amplio movimiento de actuación conjunta para conseguirlo

nuestra voluntad por lo tanto es impedir que la lomce

es impedir que atente contra nuestras competencias en materia de educación reconocidas en el estatuto de autonomía nuestra decisión y así lo ha manifestado con rotundidad la propia consejera cristina uriarte y yo mismo recientemente como usted ha recordado

pero no vamos a actuar con estridencias ni con nerviosismo

intentándolo hacer de forma consensuada vamos a intentar dotar de tranquilidad a la comunidad educativa vamos a intentar garantizar la actuación con la mayor inteligencia posible con la máxima concertación y firmeza bide honetan

o hacerlas yo en representación de todo el gobierno tenemos que ser capaces de acordar el diagnóstico sobre los aspectos negativos que la lomce implica para el modelo educativo vasco

bat gure partaidetzarik gabe garatutako proiektu bat da el anteproyecto se ha planteado sin la participación de las comunidades autónomas

se han obviado las objeciones del consejo de estado este proyecto se ha aprobado en el consejo de gobierno español con el único aval del partido popular es un proyecto de autor un proyecto que nace muerto porque nace sin consenso segundo el anteproyecto irrumpe claramente en las competencias que euskadi tiene para decidir sobre el uso de las lenguas oficiales establece un tratamiento de jerarquía para las lenguas oficiales de tal forma que el estado prioriza el castellano

a la línea de flotación de nuestro sistema educativo y de nuestra identidad cultural gure sistemak urte guzti hauetan eredugarria dela erakutsi egin du hizkuntza arloan

plantea un sistema de evaluación que conlleva el control total del currículo de las materias troncales y vacía de contenido el espacio propio autonómico vasco el estado se reserva en su totalidad los criterios de evaluación

quedan reducidas como usted decía a meras delegaciones los centros pierden atribuciones en materia de evaluación en cuanto a la capacidad de decidir sobre las titulaciones del alumnado

cuando en europa se ha demostrado que resulta más eficaz dotar de mayores atribuciones a las administraciones más cercanas a la ciudadana al ciudadano casualmente los países que presentan mejores resultados educativos como finlandia se caracterizan por ofrecer a sus instituciones locales una capacidad manifiesta del orden del noventa por ciento aproximadamente

es contraria a las recomendaciones internacionales en sexto lugar comporta un grave riesgo de retroceso para la formación profesional vasca

no mejora el funcionamiento actual de nuestros programas de cualificación profesional que ya tienen una duración de dos cursos y están orientados a favorecer la continuidad del alumnado y no a obtener un mero título inicial

se promueve la desregulación del funcionamiento del centro docente y se suprimen las facultades decisorias del consejo escolar como órgano de participación en el sistema educativo los centros educativos pierden capacidad de decisión sobre los directores de los mismos a favor de la administración educativa

la ley promueve un sistema educativo segregador que se contrapone al modelo vasco inclusivo e integrador basado en la igualdad de oportunidades la equidad y la calidad

supone un retroceso de más de veinte años en el desarrollo alcanzado gracias a nuestro sistema educativo nos

de los más torpes de europa y eso no lo vamos a consentir porque nos estamos jugando el futuro de euskadi permitan ustedes haber recordado por mi parte

como reflexión de este gobierno sobre lo que son las

los propósitos del gobierno vasco los propósitos que queremos compartir para impedir la aplicación de la lomce en la comunidad autónoma del país vasco euskadi

badira beste gobernu batzuk la consejera catalana de educación contempla la insumisión

lo que nosotros le pedimos desde el grupo de euskal herria bildu es que usted no aplique aquí

la sociedad vasca y lo que están pidiendo los agentes educativos decía anteriormente que quería escuchar esta mañana de su boca que

responsabilidad política e institucional de un nivel determinado y usted

en legislaturas anteriores también en el ámbito de la educación y no creo que ante determinadas amenazas haya escuchado de usted en legislaturas anteriores planteamientos como el que usted defiende en estos momentos pero en todo caso

nos corresponde intentar trabajar juntos por encima de las legítimas diferencias pero haciéndolo con el propósito de que nuestra función sea generar

sobre todo en esta materia en la comunidad educativa ez geldirik egoteko agirrezabala jauna justu kontrakoa da gure jarrera lasaitasuna behar dugu

nuestro sistema educativo se ha forjado en el acuerdo y en el pacto educativo por ello

utilizaremos toda nuestra capacidad normativa para preservar nuestro modelo educativo aunque ellos suponga si es preciso esquivar

siempre y cuando contemos con el apoyo mayoritario de este parlamento y de la mayoría de la comunidad educativa

edo ez dugu egingo tenemos mucho camino que recorrer tanto como el que hemos recorrido hasta ahora lo sensato es seguir trabajando

actualmente este es un proyecto del gobierno español no menos pero tampoco más tenemos que esperar a que se apruebe la ley y ver en qué términos se aprueba finalmente y a partir de ese momento además de todo el trabajo realizado hasta entonces a partir de ese momento aplicaremos insisto toda nuestra capacidad normativa para defendernos e incluso para esquivar su aplicación akordioa kalitatea

tres pilares sobre los que construiremos la mejora en nuestro sistema educativo no es de recibo y comparto con usted

nos vendrá muy bien para españolizar euskadi o para que aprendamos como usted reflejaba quién es agustina de aragón

recentralizadora de autor y con claras connotaciones ideológicas y políticas y por último

una tranquilidad basada en la certeza de que este gobierno continuará trabajando y utilizando

a su alcance para preservar la calidad y el buen nivel del sistema educativo vasco propio un sistema educativo que tiene su pilar fundamental

muchas gracias presidenta señor lehendakari permítame comenzar este turno en la tribuna para hacer un nuevo llamamiento a todas las mujeres agredidas

ámbito familiar laboral o social para que busquen ayuda porque pueden salir de esa situación nunca es suficiente insistir en este llamamiento

y desde las instituciones no podemos dejar pasar ni una sola oportunidad de repetir este mensaje mi grupo

no quiere despistarse con los contextos en los que se producen esas situaciones de violencia sabemos que afecta a todo tipo de mujeres con independencia de su raza su procedencia su situación económica ideológica o religión sabemos también que hay casos de especial vulnerabilidad por el contexto social

que no es más que la sociedad cierra los ojos ante determinadas realidades pero hablamos de una violencia incrustada que no cesa

eso es cierto porque la hemos puesto en nuestra agenda política y hemos avanzado en medidas para

con todo es evidente que no es suficiente señor lehendakari mi grupo está convencido de que usted como el resto de la cámara estamos comprometidos en mejorar

y atención a las víctimas de violencia de género pero el motivo de esta interpelación es que creemos que su gobierno ha adoptado una serie de medidas que no son acertadas

su gobierno justifica esa desaparición por el fin de la amenaza terrorista que tantos esfuerzos en todos los ámbitos ha robado a esta sociedad

permite utilizar esos conocimientos especializados en atender a las mujeres que sufren la violencia de género

son profesionales preparados para detectar riesgos evaluarlos y establecer medidas de protección adecuadas a cada situación la utilidad del procedimiento se ha demostrado en el caso de terrorismo y se ha demostrado también útil

de españa en relación a la violencia de genero se está pensando en extender también la necesidad de vigilancia policial a los maltratadores

lo que supondría un incremento en las funciones asignadas hasta ahora a ese colectivo pero también nos parece equivocada la decisión de integrar la dirección de atención a víctimas de violencia de género en la dirección de emakunde

entre las tareas de protección y las de atención se ha demostrado eficaz en materia de terrorismo y entendemos que esa experiencia debe ser extendida a esta otra violencia que últimamente nos azota con especial crudeza

unificada a través de la dirección de atención a víctimas de violencia de género euskadi contó así por primera vez con un órgano que aunó normas y los recursos que gestionaba ayudas económicas

la atención telefónica veinticuatro horas las políticas policiales de prevención y protección y la gestión de los expedientes

que intervenir tanto en educación como en lanbide se creó por tanto

de todos sus problemas sin embargo usted ha optado porque la dirección de atención a víctimas se adscriba a emakunde desde nuestro punto de vista al instituto de la mujer le corresponde en esta materia la planificación de las políticas trasversales de igualdad

que hagan imposibles situaciones de dominio por razón de género pero no creemos que emakunde sea el instrumento con el que actuar en las situaciones de violencia que se están dando y así se entiende también en otras comunidades autónomas donde

se llevan por un lado y la actuación de atención integral a las víctimas por otro

que se activó en la pasada legislatura debe tener un recorrido para que se demuestre su eficacia a medio plazo perfeccionando los recursos pero con una atención integral como ocurrió con las víctimas del terrorismo se ha puesto de manifiesto a su vez en diferentes comparecencias ante la comisión de derechos humanos igualdad y participación ciudadana

que se asumían las mismas funciones que se realizaba por la dirección de atención a víctimas de violencia de género para luego afirmar

un proceso de trabajo del que saldrá la completa articulación y reintegración de dichas funciones en los departamentos competentes del gobierno vasco así emakunde ha recogido por escrito y entregado entre el consejo de dirección de emakunde que la función principal que va a realizar emakunde es el impulso de la igualdad en todos los ámbitos y la incorporación en todas las políticas

que ha de procederse adecuarse a la distribución competencial y a la capacitación para la prestación de los servicios y así la atención a las mujeres de forma presencial

los y las profesionales con formación adecuada y de los entornos más cercanos es decir desde las administraciones locales y forales también señala que a de procederse a reintegrar otros recursos y servicios como las ayudas económicas de pago único el servicio atención telefónica veinticuatro horas satevi o el servicio asistencial a víctimas sav

con anterioridad a la creación de la dirección de atención a víctimas de violencia de género esto es en los departamentos del gobierno competentes en materia de servicios sociales

y en departamento de justicia el sav también

para mujeres víctimas de violencia pero esta gestión integrada se considera que habrá de realizarse desde un servicio

sino una colaboración asesoramiento o atención a las y los trabajadores sociales a fin de facilitarles las gestiones con todos los departamentos implicados es decir la propuesta de emakunde ubica este servicio en el departamento competente en materia de servicios sociales eso pone en evidencia claramente que no se está pensando en que la dirección de emakunde realice todas las funciones

sino que se está pensando en distribuir entre los diferentes departamentos del gobierno vasco antes mencionado estas funciones

que distribuyó en el último consejo de dirección de emakunde y voy más allá indicó en dicho escrito que para la coordinación de todos ellos

esta organización lo mismo que ya se ha realizado alguna otra modificación

por los propósitos de su gobierno en relación a las medidas para afrontar de forma integral la lucha contra la violencia de género muchas gracias eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora sánchez si es el caso

sobre lo que puedan ser los servicios recursos

avanzar en políticas de erradicación de la violencia también sobre servicios de protección escolta que usted ha mencionado pero usted en la formulación

ahora mismo en su última intervención plantea cuáles son los propósitos del gobierno vasco en relación a las medidas para afrontar de forma integral la lucha contra la violencia de género

intervención inicial me dedique a esta visión integral

en el inicio de su intervención y es que luchar contra la violencia hacia las mujeres es una prioridad para este gobierno sin duda

la violencia contra las mujeres es un problema complejo que requiere una respuesta integral como usted plantea en su

concreta esta semana pasada hemos padecido un nuevo caso que nos ha vuelto o varios casos ya

la determinación con que debemos actuar en esta materia la respuesta

que activar cuando una mujer es agredida o es asesinada tiene que ser

y tiene que actuar sobre el origen mismo de la violencia la prevención la sensibilización a edades tempranas y la educación son claves por lo tanto para la erradicación de la violencia hacia las mujeres y desde el gobierno

de que la violencia contra las mujeres es la manifestación más grave

decimos también en las campañas que este año tienen lugar actuar contra la desigualdad como base para erradicar la violencia implica por lo tanto

que se viene haciendo y permanente con efectos a medio plazo sobre ejes de trabajo estratégicos ligados a la mejora de la gobernanza a la eficacia de las políticas públicas avanzar en el cambio de valores incrementar la autonomía yel empoderamiento de las mujeres y fomentar la sensibilización social para la erradicación de esta lacra que atenta contra los derechos humanos más elementales

de que junto a esta estrategia con efectos a medio plazo resulta imprescindible actuar en el corto plazo articulando medidas y recursos para la protección y para la atención integral a las víctimas y a ello también se le da prioridad desde el gobierno en este sentido señora sánchez en respuesta específica a su interpelación

actuación sobre una respuesta integral que usted demanda

uno sensibilización y prevención y dos atención y protección de las mujeres víctimas comencemos por la sensibilización y por la prevención

sin desarrollar de forma complementaria un trabajo dirigido a la sensibilización y a la prevención de la misma supondría actuar solo sobre sus efectos pero no sobre sus causas

para que la violencia no se produzca avanzar en la visibilización de todo tipo de violencia de género y aumentar la percepción sobre el hecho de que este tipo de comportamientos son

es una línea prioritaria de trabajo para este gobierno por eso el esfuerzo de este gobierno desde hace ya tiempo se viene centrando en la sensibilización social también

hoy somos una sociedad más concienciada y más comprometida en contra de la violencia hacía las mujeres gracias a la sensibilización social sobre esta materia impulsada desde no solamente este gobierno sino que lo digo y lo reitero gobiernos anteriores en este sentido se viene trabajando desde hace años

se está trabajando en la sensibilización de las y de los adolescentes a través del programa beldur barik esta misma semana se ha aprobado el decreto de modificación de la comisión begira en este mismo sentido programas e iniciativas que están dando sus frutos y que demostrarán su eficacia en el futuro de las nuevas generaciones

en esta materia nunca se alcanza el objetivo de un trabajo el objetivo es insisto un trabajo diario que exige evaluar e impulsar las actuaciones en marcha

y en relación también a su pregunta en cuanto a una respuesta integral le anuncio nuestra determinación de avanzar en la construcción de un registro integral único de datos en materia de violencia contra las mujeres pero

nos ocupa el ámbito educativo la formación en perspectiva de género es esencial para ayudar a entender

no sucede en el vacío ni por casualidad será una formación que capacite para atender y entender a todas las mujeres que se acercan a los servicios sociales

desde el departamento de educación política lingüística y cultura se está dinamizando la elaboración de un plan de coeducación y prevención de la violencia de género en el ámbito escolar cuyos trabajos están muy avanzados por ello

de una actuación integral anuncio como primicia ante este parlamento que el próximo día veintiuno de junio

por la educación no sexista se presentará un programa de coeducación y prevención de la violencia de género en el ámbito escolar

de los centros educativos y de los agentes sociales en cuanto al ámbito de la atención y de la protección dentro de lo qué es ese planteamiento de respuesta integral

en una situación de violencia y también a menores y familiares dependientes de ellas la respuesta integral señora sánchez por lo tanto exige un alto grado de coordinación que abarca así lo que usted planteaba casi prácticamente en su intervención

la respuesta educativa la inserción laboral y el acceso a la vivienda y lo estamos haciendo señora sánchez euskadi ha sido una comunidad pionera en el trabajo en común entre diferentes instancias

de defensa contra la violencia hacía las mujeres en este sentido quiero recordar que fuimos los primeros en poner en marcha el acuerdo interinstitucional

a mujeres víctimas de maltrato doméstico y de violencia sexual y este acuerdo interinstitucional ha venido funcionando con eficacia gracias a la puesta en marcha

respuesta integral sensibilización prevención atención y protección de las mujeres víctimas son por lo tanto los ámbitos de trabajo de este gobierno si su preocupación señora sánchez es fundamentalmente la protección y sobre esa cuestión

respuesta más concreta no tengo ningún problema en ofrecérsela en la segunda intervención eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

bueno señor lehendakari con todos mis respetos

sus explicaciones pero sigo sin ver todavía muy claro cuál es la organización que se

llevar a futuro en relación en todo lo referente a la atención a las víctimas de violencia de género lo que yo sí veo muy claro

llevaba una coordinación evidente de todos los servicios que hemos estado mencionando una gestión unificada de todos ellos y no veo

desde la dirección de emakunde yo le agradezco señor lehendakari que haya reconocido el buen trabajo realizado por la dirección de atención a víctimas de violencia de género en la legislatura anterior pero yo creo que es contradictorio decir que se ha efectuado un buen trabajo

hacer desaparecer esa dirección de atención a víctimas sin que vea claramente que todas las funciones que realizaba esa dirección las haya asumido

la dirección de emakunde y la propia dirección de emakunde ya lo está poniendo de manifiesto

donde dice que para la mejor coordinación de todos los servicios considera que es necesario tener que crear un órgano ad hoc yo también estoy de acuerdo

la sensibilización y la protección en víctimas de violencia de género

importantísima las funciones que parece que va a realizar emakunde van a ser la de coordinación de planes y acciones que es para lo que

creo que está asumiendo las funciones que antes realizaba la dirección de atención a víctimas lo cual puede suponer a nuestro juicio un retroceso del camino recorrido en la protección a las víctimas de violencia de género en nuestra comunidad autónoma a ello hay que añadir la desaparición por otro lado de la unidad de acompañamientos de la ertzaintza que realizaba contra vigilancias y se va a llevar labores a las comisarías con la argumentación de que conocen mejor el entorno en que se mueve la víctima

y se ha firmado por la consejera de seguridad ante la comisión de derechos humanos de igualdad y participación ciudadana

el enfado de los componentes de la unidad de acompañamientos que manifestaron en los medios de comunicación al no reconocerse por la consejera el tiempo y el esfuerzo realizado por el gobierno vasco en la especialización de estos agentes en la materia

todos esos servicios a las comisarías y la va a coger el ertzaina que esté

en la comisaría sin que conozca todos los expedientes y cuando se muevan esas víctimas a otras comisarías que no sean la suya habitual

no conocerán el expediente de esa víctima entonces yo creo que eso es perder eficacia respecto del modelo que nosotros teníamos

como el policial la violencia de género se marque como una prioridad real en todo momento

y además la adscripción de la dirección de atención a víctimas de violencia de género dentro de la consejería de interior y la posibilidad de marcar directamente las políticas

ha supuesto un punto de inflexión tanto en el ámbito de la seguridad como en el ámbito de las relaciones de coordinación y acuerdos con el resto de ámbitos incluso el judicial todo ello nos lleva a ver que lo que se está produciendo es que desaparece la dirección de atención a víctimas va a desaparecer la unidad de acompañamientos sin que esté claramente recogido va a ser la organización a futuro respecto a lo referente a las víctimas de violencia de género

en los últimos momentos tenemos que tener muy claro que tiene que ser una máxima importante de las instituciones públicas todo lo referente a la violencia de género

víctimas la realice desde otro departamento pero que salga de una forma unificada toda la gestión de todos estos servicios por eso le volvemos a insistir en que se replantee esa organización lo mismo que ha realizado alguna modificación de estructuras en otros departamentos nada más muchas gracias

ha pretendido decirme en su segunda intervención no me he referido a la dirección de víctimas usted me preguntaba por la respuesta integral

y yo le he insistido en que la respuesta integral exige un alto grado de coordinación que abarca la protección policial el asesoramiento jurídico la asistencia psicológica las prestaciones económicas la respuesta educativa la inserción laboral el acceso a la vivienda y no me he referido a la dirección de atención de víctimas sino que he hecho el reconocimiento

y no solo del gobierno anterior sino de los gobiernos anteriores en relación a lo que es la concienciación sensibilización y actuación en relación a esta materia en todo caso sí quiero decirle que a mi modo de entender la dirección de víctimas

hace referencia la propia dirección de víctimas no gestionaba la protección ese es un tema policial no era la dirección la que gestionaba la protección

la organización por el modelo de este gobierno para avanzar en las políticas de igualdad

unificar en emakunde todas las funciones relativas a las políticas de igualdad y la coordinación de todas las iniciativas y políticas dirigidas a erradicar la violencia contra las mujeres

en las últimas décadas modelo que había demostrado su eficacia con el apoyo y el compromiso de todos los colectivos femeninos la violencia contra las mujeres tiene su origen

y es por eso por lo que entendemos que debe existir una única política que atienda a ambos aspectos una única política marcada

emakunde el objetivo final es reforzar las políticas de igualdad porque así contribuiremos a erradicar la violencia

ha de ser atendida por las entidades competentes para ello como ocurre en las demás circunstancias de la vida de las mujeres aun cuando las causas de su situación tengan raíces

quiero señalarle a este respecto que se mantienen todos los servicios de atención y de protección de las mujeres y además se mejora en efectividad los servicios de protección que da la ertzaintza ni han variado ni van a mermar

y de contra vigilancia en función del nivel de riesgo quiero señalarle además que todos los recursos siguen vigentes la prioridad para este gobierno no es centralizar los recursos sino mejorar su calidad precisamente en los lugares en los que se atiende a las personas nuestra preocupación es la mejora de los recursos destinados a la atención integral

y a la capacitación profesional esto significa que

reintegrando los recursos y servicios como las ayudas económicas de pago único y el servicio de atención telefónica veinticuatro horas o el servicio de asistencia

a los departamentos que los prestaban con anterioridad a la existencia

por último esta apuesta implica a avanzar en la gestión integrada de las ayudas de los recursos y de las prestaciones de que dispone el gobierno vasco para mujeres víctimas de violencia

garantizan insisto la prestación de los servicios de protección a todas las mujeres víctimas de violencia de género

en estos planes de reestructuración se marca la propuesta para que el servicio de contravigilancia que realiza la unidad de acompañamiento se siga realizando en coordinación

y violencia domestica se llevará a cabo en toda su integridad desde los grupos especializados existentes en cada una de las comisarías prestando de esta forma un mejor servicio de protección puesto que la medida busca incrementar la seguridad ofrecida

tienen un mayor conocimiento del entorno físico laboral y personal de las víctimas y de sus hijos e hijas y de los agresores lo que facilita la ejecución

lehendakari sabe que desde el inicio de esta legislatura hemos estado muy interesados preocupados por saber cuál era el objetivo de déficit de su gobierno hicimos alguna iniciativa

con posterioridad y en los últimos días semanas se han producido algunos acontecimientos que obviamente deben de ser considerados para seguir abordando

la de poder conseguir que el objetivo de déficit del año dos mil trece sea un objetivo de déficit similar al del año dos mil doce que como usted sabe

sabiendo como ya indicamos en su día que el que estaba planteado por el gobierno de españa del cero coma siete por ciento para este año no era un objetivo

convenido por ambas partes por el gobierno de españa y el gobierno vasco si no solamente era una cifra de referencia del propio gobierno de españa

la comisión europea ha flexibilizado el déficit incluso le ha sorprendido al propio gobierno de españa que tenía una previsión del seis coma tres por ciento o que es

la comisión europea ha permitido que se fuera el seis coma cinco dos décimas más

a nivel general hemos tomado una posición porque hemos planteado al gobierno de españa que esa flexibilización del déficit

para cumplir con el tres por ciento en el año dos mil catorce se pudieran repartir al cincuenta por ciento entre el gobierno de españa y las administraciones autonómicas estamos ahí en un debate en una discusión que

porque además a esto se ha incorporado algo que yo calificaría de bochornoso que es el espectáculo que ha dado el gobierno de españa con las comunidades autónomas gobernadas por el partido popular donde han planteado un sistema asimétrico de reparto del déficit además asimétrico no se sabe bajo qué criterio si sobre el esfuerzo fiscal la competitividad

no se sabe en base a qué criterios pero incluso

que allí nadie estaba de acuerdo con la propuesta que hacía el gobierno ya incluso con enfrentamientos entre comunidades autónomas del propio partido popular bueno en todo ese maremágnum y

estamos iniciando unas negociaciones entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista buscando un acuerdo en el país vasco usted sabe que los ingresos son fundamentales para poder hacer una política de gastos que contemplen

económica ese mantenimiento de los servicios públicos etcétera en fin todas esas políticas que son necesarias

precisamente por esta importancia añadida en este momento importante en el que estamos negociando entre las dos formaciones políticas es decisivo saber cuál es el objetivo de déficit que tiene su gobierno que diga una cifra de ese objetivo de déficit y saber si la podemos compartir o si usted quiere que la comparta señalando cuál es esa cifra

aquellas comunidades que precisamente han cumplido los objetivos que tenían establecidos y no me estoy refiriendo en este caso a cataluña como alguno de manera interesada ha pretendido hacerlo sino precisamente a las comunidades presididas por el partido popular mantengo hoy la misma opinión al respecto me pregunta en todo caso sobre los objetivos del gobierno que presido también he sido claro

además de recuperar la buena gestión de las cuentas públicas trabajar para que en el horizonte del año dos mil dieciséis volvamos al equilibrio presupuestario y todo ello garantizando la sostenibilidad de las políticas sociales e impulsando la reactivación económica hay un matiz

la relajación del déficit es entenderla como ingresos extraordinarios y ustedes han planteado también sobre hipotéticos ingresos que yo lo he mencionado en numerosas ocasiones ustedes han planteado también en relación a lo que pudiera ser la aplicación de la capacidad de endeudamiento que es capacidad de endeudamiento

ustedes lo han interpretado también cuando yo he planteado esta cuestión como ingresos virtuales pediría por lo tanto que nos ajustáramos a lo que es la realidad y es que optar a la mayor flexibilización posible del déficit que es lo que haremos y para lo que reivindicamos una comisión bilateral como nos corresponde a la comunidad autónoma

es intentar aprovechar esta oportunidad que no la desperdiciaremos eskerrik asko

lehendakari dice usted que no sabe qué cifra defenderá yo le ofrezco una

su consejero ha hablado de estar en el uno coma dos una décima arriba una décima abajo yo creo que el uno coma cinco por ciento habiendo cuenta de que cada décima son sesenta y cinco millónes de euros

para hacer algunos planes de importancia sería necesario que

yo creo que sí podemos hacer un consenso

que se celebre esa reunión bilateral en un camino de negociación con el gobierno español intentando que haya una interpretación correcta de lo que son las comunidades cumplidoras como lo es la comunidad autónoma del país vasco y en el cumplimiento del objetivo del déficit desde este gobierno no desaprovecharemos esa oportunidad en toda la máxima capacidad que se nos presente para

negociación bilateral se sustancie en el marco de la comisión mixta del concierto por cierto señor prieto sí le agradecería de la misma manera que agradeceré todo el apoyo que desde el partido socialista de euskadi venga

compañeros socialistas catalanes por ejemplo y que nos está también poniendo en la picota en otras comunidades y que definen como privilegio

entendería también que tuviéramos un planteamiento claro de lo que es la aportación del cupo de la comunidad autónoma del país vasco en ese concepto en esa interpretación

está fijando toda su intervención de manera absolutamente solidaria con lo que es

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi tenemos que hablar con propiedad tenemos que hablar de violencia machista y desde ese enfoque plantear las políticas para erradicarla de nuestras vidas

que es antinosotras sin embargo ustedes no ven este sistema como responsable de la opresión de las mujeres y por mucho que elaboren políticas de igualdad

no pongo en duda su empeño por erradicar esta lacra

que está vulnerando de manera sistemática nuestros derechos por el simple hecho de ser mujeres es imprescindible cambiar el rumbo de estas políticas

tenemos que atajar el problema de la violencia machista de raíz no para realizar acciones posteriores ante desgracias como la que la semana pasada o esta semana hemos tenido la ocasión de presenciar algo falla es evidente señor urkullu y ante esta lacra tienen que replantear las políticas

otras dos mujeres asesinadas esta semana en bilbao sin contar todas las víctimas mortales en lo que llevamos de año hemos asistido esta semana a las continuas referencias de los medios de comunicación a la nacionalidad de las fallecidas

al parecer prostitutas pues bien si lo que de manera morbosa se publica

es necesario por encima de todo poner las

porque la violencia contra estas mujeres es un problema social estructural y porque si eres mujer inmigrante y además prostituta tienes mayores probabilidades de sufrir violencia

la etnia el género la clase social que es necesario analizar y actuar elementos como la procedencia o el color de la piel indican mayor vulnerabilidad e indefensión

luchando contra su estigmatización social pero dando voz y protagonismo a las prostitutas

el camino y los pasos a seguir es clave destacar

de hecho las estadísticas por violencia machista no recogen las muertes de mujeres que ejercen la prostitución a manos de sus clientes por la ridícula razón de que no existen lazos de afecto entre ambos

la violencia contra las mujeres tiene múltiples representaciones y que el hecho de no plantearlo

desde euskal herria bildu emplazamos al gobierno vasco a diseñar con carácter inmediato un plan integral de violencia machista que impulse políticas de prevención pero fundamentalmente de coeducación

sin condicionarlas a la interposición previa de denuncia y que promueva el fortalecimiento y el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres que han sufrido situaciones de violencia machista

las políticas que se vienen dando desde europa y que ustedes aplican aquí desprotegen a las clases populares reduciendo las prestaciones sociales los servicios de cuidados desregularizando el mercado laboral aumentando las jornadas laborales y que en definitiva contribuyen agudizar esa violencia estructural contra las mujeres

que presentarán el día veintiuno desde luego si la prioridad

sean responsables con la ciudadanía entiendan que no son suficientes
mientras tanto los hijos sanos del patriarcado seguirán matando eskerrik asko

benetako konpromisoa behar da siento decirle señora urrea que no he encontrado este espíritu no en su intervención de hoy

matiz pero no he encontrado ese espíritu en sus palabras de ayer y recogidas en los medios de comunicación en una semana tan dolorosa está fuera de lugar que una representante de este parlamento señora urrea pueda afirmar

no es de recibo porque no es cierto y porque esto es justo lo contrario de lo que nos corresponde hacer como representantes políticos

es la antítesis de la sensibilización que propugnamos va en la dirección contraria de la actuación integral estructural

y solidaria para erradicar la violencia contra las mujeres que nos corresponde impulsar en política señora urrea no vale todo como parece que a usted le vale

en política no vale todo existen unas líneas rojas de ética política y parlamentaria que no se pueden traspasar

y vuelvo a citar textualmente de contribuir a la violencia estructural contra las mujeres no se lo acepto y le pido que lo retire y si no lo hace

pero además de ser una infamia no es cierto usted debería de saber que euskadi lleva ya muchos años muchos aplicando medidas y protocolos en favor de la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres no nos venga a dar lecciones señora urrea

qué plantea usted una mesa de trabajo que evalúe las políticas actuales y plantee propuestas eso es todo

anderea muchas gracias presidenta lehendakari

bien señorías la justicia es cara y hay que pagarla y euskadi quiere participar

de las tasas judiciales esta es la posición real del gobierno parece ser la posición real del gobierno vasco son palabras textuales

res pública que como todos ustedes saben se difunde entre los profesionales del derecho y eso es lo que ha ratificado usted recientemente señor consejero que a respuesta a una pregunta parlamentaria

desfavorable pero eso sí vamos a reclamarlas y también en otra entrevista este domingo matizando esa respuesta señalaba también que estemos de acuerdo o no con la ley

es decir no nos gustan pero nos vienen estupendamente bien sus consecuencias me opongo pero me aprovecho queremos recaudar y de paso como quien no quiere la cosa consagramos una justicia que depende fundamentalmente de la tarjeta

tarjeta aquello que hablábamos recientemente de una justicia para ricos los socialistas vascos

en sede parlamentaria no se fijen posiciones en entrevistas qué es lo que va a hacer en este sentido el gobierno porque realmente el único grupo que apoya al gobierno el grupo parlamentario de los nacionalistas vascos todas las semanas unos esfuerzos importantes para poder salvar votaciones para evitar esa

en minoría parlamentaria y muchas veces para salvar esas votaciones se suscriben acuerdos que

del gobierno en el arranque de esta legislatura consejero le recuerdo que usted seguro que lo recordará concretamente en el segundo pleno este parlamento se pronunció de manera contundente

que advertíamos que ponía en riesgo el derecho a una tutela judicial efectiva fue una iniciativa de urgencia para que este parlamento hiciera lo que en ese momento estaba en su mano para impedir que determinados colectivos quedarán excluidos de este derecho y no resultó baladí porque en realidad

gracias a la presión de esta institución de otras instituciones además de la presión de numerosos colectivos sociales ha rectificado alguna de las tasas previstas inicialmente pero esto tampoco ha servido de nada de hecho lo que pasa es que no se ha escuchado el mensaje de fondo las tasas judiciales limitan derechos

tienen que garantizar esos derechos saben ustedes que hace apenas diez días en la presentación de la memoria del tribunal superior de justicia del país vasco

del deterioro que va a sufrir la calidad de la justicia entre otras razones por estas tasas y dijo textualmente las tasas no están bien calibradas habrá que saber parar este mecanismo antes de que nos inunde y nos ahogue a todos

del continente han pedido expresamente la retirada de esta ley por los mismos motivos el fiscal general del estado también considera las tasas

promovido por partidos y asociaciones civiles los juzgados de lo social en este país en euskadi han realizado una interpretación laxa de la ley para evitar que los trabajadores tengan que pagar tasas en la jurisdicción social

en febrero y luego volvió a recurrir el real decreto ley en mayo y mientras tanto nuestro gobierno

mientras tanto nuestro gobierno diciendo que la justicia es cara y que hay que pagarla y qué es lo siguiente que vamos a tener que pagar acaso no es cara la educación acaso no es cara la sanidad

la cumbre social vasca se presentó en este parlamento y este organismo

se ha dirigido también a esta cámara para solicitar que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales

de inicio de la legislatura en el que por cierto no acordamos que el parlamento interpusiera recurso de inconstitucionalidad en parte

de confianza al gobierno un voto de confianza al gobierno como garante de los derechos de la ciudadanía vasca una confianza que

no ha habido una acción ha habido más bien una inacción del gobierno en este sentido

supla esta inacción del gobierno e intervenga para

a los ciudadanos vascos en este asunto nosotros asumimos ahora

petición y promoveremos que se presente el citado recurso lo haremos consejero porque

dice rechazar la ley mientras pone la calculadora en marcha

no me gustan pero pone la mano como un cazo y entre tanto y tanto de vez en cuando hay incluso alguien que abre la boca sin límites

los gobiernos socialistas de españa consejero impidieron el pago de las tasas para acceder al derecho constitucional de buscar el amparo de la justicia

ante toda medida que afectaba a los derechos fundamentales de los ciudadanos vascos

dice unas veces unas cosas otras veces otras y mientras tanto

consejero ustedes se han arrogado el lema de primero las personas pero la realidad no está demostrando eso la realidad demuestra que en su cabeza no están las personas ni las instituciones que

por eso les instamos a que no miren la tarta

justicia a los usuarios ciudadanos que son usuarios de la justicia

en los jueces la protección de esos derechos que se sienten vulnerados a esos ciudadanos a esa gente que tiene que desistir de hacer una reclamación de cantidad por humedades porque le cuesta más la salsa que los caracoles como usted

es una parte de la solución pero no es la solución tiene un límite le instamos consejero a que hagan valer

que ejerzan esas posibilidades de nuestras instituciones de autogobierno que como hizo el anterior ejecutivo vasco eleve el recurso de inconstitucionalidad en este caso

su derecho a la tutela judicial efectiva y que quieren que sus instituciones hagan lo posible para recuperar

rechazar rotundamente esas declaraciones de la viceconsejera y por eso queremos reclamarle consejero claridad queremos que nos diga qué es lo qué pretende hacer y concretamente la pregunta

cuáles son las intenciones del gobierno para garantizar en euskadi la tutela judicial efectiva estando en vigor la ley de tasas judiciales

su respuesta consejero gracias eskerrik asko gallastegui andrea